ya me parecía a mí señor agirrezabala que no era propio de usted marcharse sin contestar

porque sino no sé con quién íbamos a hablar digo porque el exceso de adrenalina que le producía a usted el grito de viva la república

que lo ha hecho absolutamente ininteligible porque oiga

decir tomemos el euskera con la atención preferente que el euskera es el eje del sistema educativo vasco porque es más retórico una cosa que otra por qué resulta que una proposición no de ley resulta ser una

señoría como todas o sea lo que no podemos es ir a construir la ciudad ladrillo a ladrillo desde aquí

y que conoce el valor de las palabras no creo yo que su conocimiento del euskera le impida conocerlo cómo que no es más significativo decir

implantaremos con carácter progresivo y con carácter general que impulsaremos el trilingüismo cómo que no

y otra cosa es implantar que en educación quiere decir lo que dice implantar de forma progresiva y generalizada el trilingüísmo pero claro si resulta que el objetivo de la educación exclusivo

lo cual es una perversión porque el objetivo de la educación es el desarrollo de las competencias que pueda tener cada persona ya sea monolingüe bilingüe trilingüe o mudo el desarrollo de las competencias

y que esa persona pueda tener un futuro en la vida laboral eso es el desarrollo y el objetivo de la educación

obviamente tienen que ir acompañando el desarrollo de destrezas pero oiga no es el único objetivo y usted me va a decir cómo quiere hacer usted

al menos a una lengua extranjera al menos un veinte por ciento del mínimo del horario curricular pero le diré más mire usted la escuela es que es

pero no es suficiente no se puede cargar a las espaldas de la escuela absolutamente todo no es suficiente la escuela vive en un mundo social y por lo tanto el resto de agentes sociales tienen que ayudar en ese cometido por lo tanto mire usted

porque claro tenía que dar el grito de viva la república y eso pone muy nervioso claro

mire usted si usted quiere que el sistema educativo trabaje en una lengua extranjera al menos además de las cooficiales me usted a decir a mí me va a aclarar cómo puede hacer eso el sistema educativo

a ver a ver qué quiere decir escuela plurilingüe oiga eso es lo que quiero que me aclare usted con respecto a la señora berriozabal

que hemos firmado lo que hemos firmado hemos firmado implantar

que en el ámbito educativo quiere decir eso implantar

general quiere decir empezar a generalizar eso es lo que quiere decir por tanto yo creo creo en su lealtad como partido

lo que dice esto porque yo ya he visto su enmienda a la totalidad primera pero esa es la que no hemos firmado hemos firmado esta con atención preferente al euskera cómo qué oiga como viene trabajando el sistema educativo vasco quién puede decir aquí que el sistema educativo vasco no está trabajando con una atención preferente al euskera

está trabajando con una atención preferente al euskera y en un marco flexible que respete la autonomía de los centros y la libertad de elección de las familias

en eso estamos pensando por tanto claro que habrá muchos sistemas trilingües diferentes

en una lengua extranjera con carácter general en todo el sistema educativo para que nadie sea tratado de manera desigual

oiga mire usted si el bilingüismo no es pensamiento uniforme y está en todos los centros porque el sistema educativo vasco es bilingüe según todas sus declaraciones

sistema de pensamiento único habrá diferentes trilingüismos pero aquí lo que queremos obtener

el inglés preferentemente u otra lengua extranjera con carácter general se extienda esté en todos los centros educativos y para ello ustedes tienen que empezar tienen que empezar a trabajar de manera firme y desde luego no se empieza a trabajar

ni con otro tipo de políticas hay que entrar a trabajar con políticas decididas para

de una escuela bilingüe a una escuela trilingüe como país
nos lo merecemos nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

celaá solamente me dice que he

pero es que veo que lo ha entendido perfectamente habré precipitado el debate pero ha entendido perfectamente lo que he dicho señora celaá

no sé si lista o no pero lo ha entendido perfectamente por lo tanto la precipitación del debate es una cuestión que usted se ha sacado de la manga a ver usted me dice a mí que qué diferencia hay

sea el eje o vamos a darle una atención preferente pero si ustedes cuando vinieron al departamento el currículum del año dos mil ocho lo cambiaron y esta fue una de las claves que cambiaron

eje quiere decir que es el eje que pivota sobre eso y la atención preferente quiere decir que hay tres lenguas

nosotros lo planteamos no planteamos como atención preferente nosotros lo que estamos haciendo es plantearlo como eje

usted como responsable del departamento eso sí que me ha extrañado a mí y ahí sí que le he visto un poco nerviosa más de lo que estaba yo antes a pesar de lo que haya dicho

segunda cuestión dice el papel de la escuela no solo para que en el euskera tengan

es suficiente el papel de la escuela claro que sí claro que estamos de acuerdo en eso pero aquí nos toca debatir

cuál es el papel de la escuela y en el papel de la escuela en el recorrido de estos últimos más de treinta años hemos visto que no se adquieren los objetivos que en un principio se pretendían tanto desde la ley de normalización

eso ya lo sabe usted pero todavía falta mucho por conseguir y lo que falta por conseguir es precisamente en esa lengua que más necesidad tiene que menos presencial social en esta sociedad

eso ya lo sabe usted perfectamente por lo tanto nos toca eso cómo hacemos desde la escuela aquello que nos pide la ley que los alumnos y las alumnas logren las competencias necesarias al acabar la enseñanza obligatoria y en castellano en las dos lenguas oficiales incluso tercera cuestión yo creo que usted en el fondo

obviando el debate de fondo porque

usted ha insistido sobre todo en un concepto que es progresión o sea que se vaya implantando progresivamente

el sistema educativo vasco introduciendo el inglés tercera lengua o el francés

desde hace mucho mucho tiempo señora celaá desde hace mucho tiempo por lo tanto cuando yo le digo que cuando usted define esto como un paso muy significativo

nosotros no le vemos en qué se materializa eso porque

muchos centros están trabajando eso ya lo sabe usted por lo tanto no vemos

desde nuestro punto de vista si se lo decía en mi primera intervención que parece que ha sido precipitada y que usted no ha entendido

que a mayor competencia en las dos lenguas oficiales mayor competencia en la tercera lengua señora celaá eso lo ha apuntado también en su primera intervención por lo tanto si eso es así si el déficit de adquisición de competencias está en el euskera

esa es la clave desde nuestro punto de vista del debate y es lo que creemos nosotros que no se aborda aquí ese es el debate de fondo desde nuestro punto de vista y mientras no se aborde ese que sí podemos hablar de trilingüismo de

nuestro modelo de lo que nosotros defendemos lo que nosotros defendemos es alumnos

plurilingües de eso es mejor que nos sentemos a hablar antes de traer aquí estas propuestas que

a más unas declaraciones de intenciones que no a medidas concretas que hay que tomar para implantar y para conseguir alumnos

muchas gracias señora presidenta efectivamente nosotros hemos firmado esta transacción porque defendemos como hemos defendido siempre un sistema trilingüe para nuestros sistema educativo y lo defendemos

principios que hemos defendido siempre no sé por qué tenemos que reiterarlos señor maneiro porque su discurso nosotros ya lo habíamos hecho aquí años antes de que llegase usted a esta cámara

hoy firmamos esa transacción seguimos defendiendo la misma libertad de las familias

defendemos un modelo trilingüe que sea equilibrado que por supuesto reconozca al euskera y al castellano como lenguas vehiculares de nuestro sistema educativo

queremos y defendemos desde el partido popular un sistema trilingüe que responda a la demanda de las familias que responda a las necesidades que tienen ya hoy

para el futuro las necesidades de un sistema educativo que tiene que ser capaz de competir en un mercado global

queremos defender aquí pero hacerlo además defendiendo un sistema equilibrado que respete mínimos en la carga horaria del castellano del inglés ya sabemos que bildu no quiere un modelo trilingüe para nuestra educación

monolingüe en euskera donde el resto de las lenguas sean una anécdota en la escuela vasca pero nosotros no estamos con ellos

pero es verdad que hemos firmado una transacción en la que decir que el euskera tenga una atención específica y preferente no

lo que siempre hemos defendido aquí no hubiesemos firmado la enmienda que presentó el partido nacionalista vasco donde hablaba de que el euskera

queremos y creemos que además avanzamos

en el compromiso de implantar un modelo trilingüe que efectivamente luego defenderemos desde nuestra posición que sea un modelo flexible

a elegir en esa posibilidad

un modelo que supere o unos modelos que superen seguramente

de verdad afrontemos como en otras cosas también aquí un tiempo nuevo en el que un modelo trilingüe nos permita defender a todos una política lingüística en la educación vasca sin imposiciones de ningún tipo y creo que sobre esos principios que son los que defendimos siempre desde el grupo popular

nosotros desde aquí instamos aprovechando la presencia de la consejera a que se ponga en marcha con valentía sin ningún complejo y sin atender a quienes no creen

con el plurilingüismo respaldados por una mayoría en este caso

creen que es positivo para sus hijos que nuestra escuela y especialmente la escuela pública

una escuela pública que pueda abordar de verdad un proyecto trilingüe atractivo para las familias creo que eso es importantísimo

hace falta esfuerzos esfuerzos económicos también recursos voluntad política y recursos porque hace falta una específica del profesorado y hace falta tomar medidas concretas y claras para que esto se pueda poner en marcha y no se quede como una especie de declaración de intenciones en el cajón creo que ya tenemos experiencia suficiente ya tenemos exactamente elementos que ha habido ochenta y cuatro centros que vienen trabajando

los últimos cursos yo creo que

para saber que esto lo podemos impulsar al conjunto
del sistema educativo en el país vasco nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

eskerrik asko legebiltzarburua después de este debate yo me alegro fundamentalmente de dos cuestiones

se haya recogido uno de los elementos importantes de nuestra enmienda de totalidad había muchos elementos pero entendemos que uno de los elementos importantes era el reconocimiento de la necesidad de dotar de una atención

al euskera que se considere al euskera como eje que se le dé una atención preferente elija usted la palabra que prefiera

existente en la sociedad la segunda cosa que me alegra profundamente es que a pesar de llevar muchos meses

y trilingüismo no solo por parte de un grupo parlamentario

todo esto hoy ha quedado claro que met y trilingüismo no son sinónimos no es la única propuesta posible a eso me refería señora celaá cuando yo hablaba

siempre hemos dicho que no cabía la generalización en términos de exclusividad

que necesitamos seguir mejorando nuestro sistema pero que la solución no es un único modelo sea trilingüe o no

homogeneizadora que había que valorar todas las experiencias que podían ser positivas para dar pasos hacia adelante avanzar hacia el plurilingüismo pero siempre en base a un bilingüismo efectivo y real

se parece más o se acerca más a la enmienda de totalidad planteada por el partido nacionalista vasco que a cualquier otra cuestión precisamente se termina incluyendo

aquello que ustedes no querían incluir pero que finalmente han tenido que asumir para ganar

del grupo nacionalistas vascos de hecho lo único novedoso de la transaccional que hoy ustedes han firmado y que saldrá adelante respecto a otras transaccionales que se han firmado en relación a esta cuestión es precisamente esto lo que ha aportado el grupo nacionalistas vascos es decir que

sea o reciba una atención preferente que la portavoz del grupo nacionalistas vascos ha traducido o lo ha convertido en sinónimo de que el euskera sea el eje central ha dicho que básicamente es lo mismo sí

si ustedes no están de acuerdo en lo fundamental no firmen transaccionales conjuntas porque resulta que el portavoz de eh bildu ha dicho que no

mientras que la portavoz del grupo nacionalistas vascos ha dicho que por fin ha incluido que el euskera sea eje central no de esa forma diciendo que reciba
una atención preferente isiltasuna mesedez en fin yo por todas estas razones no me voy a

transaccional que ustedes han firmado los principios de upyd creo que son claros y meridianos

una época en la que hay determinados partidos políticos que se van recolocando consecuencia

está por ver qué es exactamente lo que defiende en relación a la política lingüística el partido popular está por ver muchas cosas en relación a qué es lo que defiende

esperar vamos a esperar no vamos a votar esta transaccional para ver si efectivamente el pp en este caso corrige su posición histórica en relación a la política lingüística como lo hizo en relación a garoña

cuestiones en todo caso ya digo escuchados sus discursos no parece que estén tan de acuerdo como para firmar esta transaccional nuestros discursos nuestros principios son claros garantizarse

garantizarse que el castellano vaya a seguir siendo lengua vehicular que se debe respetar el derecho a estudiar en castellano de la misma forma que se debe respetar el derecho a estudiar en euskera la autonomía de los centros la libertad de las familias y evidentemente hacer

conseguir la mejor capacitación lingüística de los profesores si se va a garantizar esto está por ver nosotros observaremos digamos desde la distancia desde la oposición no no vamos a firmar ni vamos a votar

que recoge la firma del partido nacionalista vasco que ya sabemos qué es lo que ha venido defendiendo históricamente y lo que defiende ahora en relación a esta cuestión nada más eskerrik asko

iniciativa recientemente el pleno del ayuntamiento de san sebastián aprobó instar al gobierno municipal a colocar placas conmemorativas en aquellos lugares en los que fueron asesinados las ciento dos personas que sufrieron el azote del terrorismo

una extraordinaria iniciativa planteada por el partido popular en san sebastián que nosotros hemos querido traerla aquí para ampliar esta exigencia al conjunto de los municipios vascos y españoles porque pensamos que este no es un asunto digamos puramente municipal va mucho más allá de eso y por lo tanto nos parecía interesante plantear esta iniciativa en el parlamento vasco lo cierto es que son pocos los municipios que cuentan ya con una placa o un monolito o un elemento

a las víctimas del terrorismo consideramos que esta es una medida justa y necesaria para mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo por lo que consideramos adecuado

y es esto lo que hemos pretendido con nuestra iniciativa con la que pretendemos que este parlamento inste a los ayuntamientos de euskadi y del resto de españa a colocar placas conmemorativas en los lugares donde fueron asesinadas las víctimas del terrorismo con la que pretendemos que este parlamento inste al gobierno vasco y al gobierno de españa a colaborar

en la consecución de ese objetivo y con la que pretendemos que este parlamento remita este acuerdo a eudel a la federación española de municipios y provincias vascas y a todos los municipios de euskadi en el fondo no se trata si no de completar es cierto el mapa de la memoria puesto en marcha por el ejecutivo anterior y que cuatro años después sigue sin completarse de ahí la transaccional que finalmente hemos firmado con el grupo socialista y con el grupo popular upyd cree que la colocación de placas de memoria de las víctimas del terrorismo va en plena consonancia

de diecinueve de junio cuatro barra dos mil ocho de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo que dice textualmente que los poderes públicos vascos promoverán el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y a la deslegitimación total y radical de la violencia y con el artículo cinco punto tres ley que señala que las medidas reparadoras comprenden igualmente el impulso de un conjunto de actuaciones públicas destinadas a proporcionar a las víctimas una satisfacción y restablecer públicamente su dignidad reputación y derechos así se promoverá de manera consensuada con las propias víctimas y con sus asociaciones

las iniciativas a nivel local que busquen el reconocimiento y la empatía con las víctimas del terrorismo la presencia del testimonio de las víctimas en proyectos de educación

así como otras expresiones de carácter simbólico a través de las cuales se manifieste el apoyo y reconocimiento social ético y político a las víctimas

el asentamiento de una memoria colectiva para deslegitimar el terrorismo y para recordar a quienes fueron sus víctimas inocentes es fundamental y una obligación ética y moral de las instituciones los partidos políticos

y la ciudadanía en general no puede haber no debería haber ningún tipo de excusa para aprobar esta iniciativa justa que finalmente hemos acordado con el grupo popular

a quienes agradezco su disposición a acordar y a firmar bien pensado es lo lógico

es puro sentido común se trata de recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo algo indispensable para lograr la deslegitimación plena del terrorismo y el cumplimiento de los más básicos principios democráticos morales y éticos es una obligación del conjunto

ya durante la pasada legislatura fueron varias las ocasiones en las que preguntamos al gobierno vasco por los pasos que se estaban dando en relación al mapa de la memoria

un atentado le explicamos al gobierno que esto no podía ser considerado un asunto puramente municipal y que por lo tanto el gobierno vasco debería implicarse pasados los años es obvio que queda mucho por hacer consecuencia también de la desidia del gobierno vasco ahí está

observamos ciertamente la no disposición del grupo nacionalistas vascos a firmar esta transaccional y a apoyar esta iniciativa y observamos también la enmienda que ellos han presentado su enmienda y su propuesta y su documento culminando

que defienden en esa enmienda de totalidad un proyecto un documento que lo que finalmente pretende es no culminar el proyecto original se presenta este documento culminando el mapa de la memoria

para desvirtuar la propuesta original para desvirtuar el mapa de la memoria para convertirlo en otra cosa para mezclar unas víctimas con otras para quitar importancia a las víctimas de eta ustedes pretenden

no se sepa la verdad de los hechos ocurridos señores nacionalistas o mezclando cosas que no pueden mezclarse confundirlo suficiente para que no se sepa que existió terrorismo en euskadi y qué clase de terrorismo existió nacionalista terrorismo que no tuvo ninguna justificación y que no respondió más que a los deseos de sus autores de imponer un proyecto político totalitario contra la mayoría de la sociedad ustedes han decidido el espíritu original del mapa de la memoria y por lo que observamos sin ningún tipo de consenso malas noticias ustedes pretenden diluir el terrorismo de eta en un océano de maldades para confundir

a la ciudadanía para defender la teoría del conflicto político para blanquear la historia criminal de eta para presentarla como una más de las muchas más supuestas violencias que existieron en euskadi

esto no puede casar ni va a casar con los planteamientos de upyd ni puede casar ni va a casar con los planteamientos que nosotros realizamos en nuestra enmienda de transacción en esta lo que proponemos es instar a los ayuntamientos de euskadi a que en colaboración con el gobierno vasco complete el mapa de la memoria con la colocación de hitos y placas conmemorativas en todos los lugares donde fueron asesinadas del terrorismo proponemos instar a los ayuntamientos del resto de españa a que en colaboración con el gobierno central impulsen también elementos de recuerdo a las personas que fueron asesinadas por el terrorismo en sus municipios esto es lo que nosotros defendemos como digo una iniciativa justa una iniciativa necesaria una iniciativa en defensa de las víctimas del terrorismo y de la dignidad

parlamentarios señora consejera buenos días

suficiente yo creo que rotunda y clara y poco más tendré que decir

rey felipe sexto ha tenido palabras de recuerdo y homenaje hacia las víctimas del terrorismo que perdieron su vida

y ha dicho el rey que la victoria del estado de derecho junto con nuestro mayor afecto será el mejor reconocimiento a la dignidad que merece ahí están las claves señorías

yo agradezco al señor maneiro haber traído esta iniciativa en un día tan oportuno y creo que la enmienda de transacción que firma el proponente junto con el grupo popular y el grupo socialista completa

con las víctimas del terrorismo además el rey con las víctimas del terrorismo tendrá uno de los primeros actos institucionales el próximo sábado y se lo tenemos

la enmienda de transacción ya la ha recordado el señor maneiro quiere instar a los ayuntamientos

a que colaborando con el gobierno vasco complete ese mapa de la memoria con esa colocación de hitos de placas conmemorativas en todos los lugares donde fueron asesinadas las víctimas del terrorismo está claro que por eso el parlamento vasco también hace bien

con otras instituciones impulsen también elementos de recuerdo a las personas que fueron asesinadas por el terrorismo en sus municipios y que este acuerdo sea remitido a eudel a la y a todos los municipios de la comunidad autónoma vasco

es clara y solo pueden votar en contra

no tienen claro qué es el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y las cuestiones básicas en relación con la memoria con la justicia y con la reparación

clara es una enmienda indiscutible perfectamente

y absolutamente asumible por los ayuntamientos yo espero que al igual que en san sebastián ante la propuesta de ramón gómez nuestro compañero

se abstenga y la enmienda salga aprobada muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señorías es necesario recordar que

llevó a cabo miles de atentados centenares de asesinatos en euskadi y en el resto de españa provocando

un inmenso dolor un inmenso sufrimiento a muchísimas familias y a una gran parte de la sociedad vasca y es oportuno para el debate que vamos a tener hoy recordar que esas acciones de eta no fueron casuales

no respondían a una estrategia planificada organizada

de la violencia terrorista imponer su proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la ciudadanía vasca y por eso

adelante una política de terror de utilización del terrorismo para intentar eliminar al diferente coaccionarlo amenazarlo

a todos aquellos que le plantaban cara otras organizaciones terroristas

por procedimientos ilícitos y con medios también macabros y absolutamente rechazables las víctimas del terrorismo por tanto merecen

para que nadie olvide el inmenso dolor el inmenso sufrimiento que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad y hoy es verdad que fruto de la política

del trabajo policial y judicial de la colaboración internacional del rechazo y repulsa de la inmensa mayoría de la ciudadanía al terrorismo hemos conseguido acabar

conseguiremos que eta acabe desapareciendo definitivamente y es verdad que estamos en nuevo tiempo sin actividades terroristas empeñados en consolidar definitivamente

pero precisamente también por eso es necesario que nunca olvidemos a las víctimas del terrorismo que sigamos honrándolas y recordándolas para que nunca se olvide el daño y el dolor y el sufrimiento sí pero también como como antídoto para que nadie más tenga la tentación de volver a utilizar el terrorismo como instrumento para defender sus posiciones y en este marco es precisamente en el que el gobierno socialista del que forma parte en euskadi puso en marcha un proyecto denominado mapa de la memoria

que tenía y a nuestro juicio tiene que tener como objetivo colocar en todos los lugares de euskadi donde hubo asesinados por el terrorismo

que recuerden al conjunto de la ciudadanía a las víctimas y además nos recuerden

daño sufrimiento y dolor que el terrorismo ha causado impulsamos el mapa de la memoria por justicia para evitar el olvido

para construir una sociedad ética y democráticamente decente el mapa de la memoria también respondía a lo previsto en la ley de víctimas del terrorismo que se aprobó por amplia mayoría en este parlamento en el dos mil ocho y que cabe recordar algunas cosas de las que contiene donde se dice que el futuro de nuestra convivencia

y añade que el reconocimiento a las víctimas del terrorismo no es solo un acto de justicia sino la expresión más sincera de una sociedad que no quiere revivir nunca más el sufrimiento injusto que ha padecido

reclamaba la ley que los poderes públicos promovieran el asentamiento de la memoria colectiva y que

a las víctimas del terrorismo quiero recordar

tenía este objetivo insisto que en todos los lugares de euskadi y si es posible en el conjunto de españa se recordará con hitos placas o otros elementos a las víctimas del terrorismo a todas las víctimas

pero no establecía que fuera a otras víctimas y este es uno de los problemas que tenemos hoy desgraciadamente en este debate porque algunos con responsabilidades de gobierno ignorando lo previsto en la ley de víctimas del terrorismo y el origen del mapa de la memoria

ahora pretenden que el mapa de la memoria incluya también a lo que se llama otras víctimas o a las víctimas de la violencia como ahora se viene a decir y a nosotros nos parece que ese es una equivocación que es mezclar lo que no se puede mezclar

tienen derecho a ser recordadas y que por supuesto hay que tener en cuenta sus reivindicaciones y atenderlas pero

es un mal camino hacerlo porque entre otras cosas queriéndolo o no se está permitiendo que algunos planteen la hipótesis de que

o que no asuman sus responsabilidades de ejecutar acciones terroristas ampararlas apoyarlas y justificarlas y para construir el futuro es fundamental que cada uno asuma sus responsabilidades porque sino estaremos construyendo una sociedad enferma una sociedad que olvida y es necesario mirar al futuro sí pero es imprescindible no olvidar el pasado para que no se vuelva a repetir nosotros no somos sospechosos de no querer atender

fuimos el primer gobierno que puso en marcha medidas y un decreto específico para atenderlas pero lo hicimos como hay que hacer las cosas ordenando la acción política estableciendo distancias y medidas concretas para cada caso

nos parece una terrible equivocación que ahora se pretenda trastocar permítaseme decirlo con esta contundencia prostituir el mapa de la memoria que originariamente

porque nos parece que es una equivocación aunque solamente sea porque esa intención rompe los consensos que hemos construido juntos

que al gobierno vasco y al partido que le da apoyo no le gusta que le recuerde estas cosas pero hoy objetivamente quien quiera analizarlo con un poco de frialdad

que alguien me puede decir que puede ser responsabilidad de todos pero se me tendrá que aceptar a continuación que quien más responsabilidades tiene

para que los consensos no se rompan es quien gobierna y lejos de hacer esto

que claramente han ido rompiendo los consensos que hemos ido tejiendo durante tantos años y debería reflexionar sobre su responsabilidad en esta cuestión se lo he reclamado al lehendakari en otras ocasiones hoy se la reclamo al gobierno al lehendakari también al grupo que le da

porque la mejor política también en memoria es la que se hace desde el consenso y es evidente que la política que está impulsando el gobierno lejos de ampliar consensos lo que hace es estrecharlos lejos de facilitar los consensos

y creo que ese es un mal camino nosotros planteamos

que se complete lo antes posible el mapa de la memoria el mapa de la memoria original el que pactamos juntos el que pusimos en marcha juntos con el impulso del gobierno el que consensuamos juntos y

la apuesta que contiene la enmienda transaccional que hemos suscrito con el partido popular y con upyd yo pido a todos altura de miras y responsabilidad porque sobre estas cosas hay que

con criterios y defensa de valores éticos y democráticos básicos y profundas y no estar en la oportunidad o intentar convencer a algunos para luego no convencer a nadie

hiru hilabetean berri ematera estos son por tanto los objetivos de la enmienda que presentamos

ni de blanquear ni de dar pábulo a teorías del conflicto que no compartimos y que hemos dicho claramente que no compartimos y que nuestra praxis política justifica y demuestra claramente que no compartimos creemos en una paz basada en la memoria así nos hemos comprometido en todos

desde la ley de víctimas del terrorismo de cuya paternidad también nos hacemos responsable aprobada bajo

participado también y seguimos ratificando nuestro compromiso con las conclusiones de la ponencia de paz y convivencia de la legislatura pasada que establecían claramente cuál era el suelo ético sobre el que construir la paz y la convivencia y en el que se dejaba claramente sentado que la paz tiene que estar basada en la memoria y que no estamos dispuestos

que pase valga la redundancia por el olvido por echar tierra o cal viva o cualquier otra

o disfrazar lo que aquí ha ocurrido y queremos hacerlo como hasta ahora desde el consenso político desde el respeto a las víctimas y desde el acuerdo a sus familias queremos avanzar en la construcción de la paz queremos avanzar en la construcción de una paz basada en la memoria y queremos hacerlo desde

consenso y esa ha sido la voluntad del gobierno vasco a la hora de presentar

culminando el mapa de la memoria dar un impulso a un proyecto que no avanzaba y que algunos de los firmantes de la enmienda denunciaron en la legislatura pasada al gobierno anterior que no avanzaba que no hacía lo suficiente con ese

no queremos mezclar víctimas no queremos mezclar hechos queremos reconocer y recordar a todas las personas injustamente asesinadas

y de no discriminación de las víctimas ese es el objetivo ni estamos ni hemos estado jamás en la justificación de la teoría del conflicto ni estamos

de una sociedad conciliada en base a unos principios sólidos

en no repetir errores que la sociedad española cometió durante la tan ponderada transición por algunos y cuyas consecuencias todavía cuarenta años después estamos viviendo no queremos repetir los errores queremos que las ochocientas y pico víctimas de eta

tengan su reconocimiento desde luego vamos a estar desde el gobierno van a estar desde el gobierno impulsando con los ayuntamientos con eudel ese trabajo de conclusión del mapa de la memoria también de la puesta en marcha del instituto de la memoria en los consensos también en el día de la memoria que también comenzó como decía el señor ares con un objetivo de reconocer a las víctimas del terrorismo

las relaciones entre el gobierno y la oposición en la legislatura pasada se amplió según se iban reconociendo otras víctimas a víctimas de violaciones de derechos humanos en una situación de violencia

así fue en el día de la memoria y no entendemos por qué lo que valía para eso

qué es lo que ha cambiado y quién es el que ha cambiado nada más muchas gracias eskerrik asko iturrate jauna

ez zirelako en efecto decisiones que varios municipios vascos han adoptado

han sido depuestas a la fuerza por el estado decisiones adoptadas por esos municipios en absoluta

en sincero reconocimiento a víctimas de violencia

que han recibido la única respuesta que conoce el estado el abuso de poder ante la propia voluntad del municipio no hace mucho

daba nombre a la plaza txiki eta otaegui en recuerdo a los dos jóvenes fusilados el veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y cinco la iniciativa de prohibir la nominación de la plaza venía precisamente del delegado del gobierno español en la comunidad autónoma vasca entonces

el auto consideraba que el nombre y cito vulnera el derecho al honor y la dignidad de las personas especialmente de las víctimas del terrorismo

cuando estas dos personas recibían posteriormente reconocimiento en virtud de ese decreto

las víctimas del terrorismo del terrorismo franquista de aquel estado terrorista

además de etxebarri procesos similares se siguieron tanto en zornotza como en leioa

quitar la placa de una plaza dedicada a josé miguel

cierto dirigente de eta igualmente cierto víctima mortal

víctima pues y así reconocida del terrorismo de ese que se prefiere obviar un juzgado ordenó al ayuntamiento de getxo retirar la placa que recuerda a eustaquio mendizabal txikia víctima mortal de una emboscada

así mismo al ayuntamiento de donostia se le impuso la retirada de una calle en recuerdo de mikel gardoki igualmente por la policía franquista en mil novecientos setenta y cinco ez da guztia oiartzunen ere gatazkarekin zeri ikusia zuen hildako pertsona batzuei oraitzapenerako

tratamendua izan duten azalduz porque la persecución de la memoria no se queda en la mera destrucción de hitos o elementos memorialísticos

en la cual representantes de esa fundación de víctimas de violencia de estado nos explicaban que además de la denegación de los derechos a la verdad y a la justicia

negando ahora el derecho al mero reconocimiento con el rechazo a abonar indemnizaciones que además anteriormente reconocidas denunciaban así pues una tercera victimización ya que el motivo para denegarles esos derechos es que quienes murieron fueran presuntamente miembros de eta miembros o simpatizantes de partido políticos

criminalización de las víctimas del estado que en cierta manera da por bueno da por bueno el hecho principal de victimización es decir el ataque

pero sí al menos quiero apuntar una conclusión de todas

que incluya todo el mapa del sufrimiento una voluntad sincera de la que eh bildu participa hablamos de dos varas de medir

hablamos de una ley del embudo por la cual se recuerda lo mío por decreto y se olvida lo tuyo por imperativo judicial

sino es por reacción policial porque tu relato es inoportuno además delictivo aún exteriorizarlo la ley hecha para albergar la trampa la administración de la parcialidad de la arbitrariedad y de la injusticia

hecha con un parche en el ojo una iniciativa que no solo dificulta esa imagen global sino que se basa en la represión de la fotografía completa de la memoria en la detención de quiénes impulsan legítimamente visiones diversas alternativas de la memoria en la persecución de esas expresiones de la autonomía local que llevan a reconocer y reconocer a víctimas de todas

tengo que decir que cuando presenté esta iniciativa di por hecho que se aprobaría en el pleno del parlamento vasco

la apoyaría el conjunto de los partidos políticos

evidentemente no esperaba el voto de eh bildu en absoluto pero sí que pensaba que podíamos aspirar a llegar a una transaccional los grupos políticos democráticos para homenajear a las víctimas del terrorismo pero lo cierto es que no hay manera no hay manera de que de este parlamento salga una propuesta favorable a las víctimas del terrorismo que no mezcle

con otras víctimas o con otras supuestas víctimas no hay manera de centrarnos en la realidad política que supone la existencia de las víctimas del terrorismo no hay manera de que las víctimas del terrorismo

por este parlamento no hay manera otra vez las víctimas del terrorismo van a observarnos y se van a sentir olvidadas maltratadas

y ciertamente otra vez como consecuencia de la actitud absolutamente impresentable del partido nacionalista vasco que el partido nacionalista vasco no ha defendido la teoría del conflicto político nos viene a decir el portavoz cuando básicamente no ha hecho otra cosa bien con acciones bien con omisiones o bien con declaraciones esta es la realidad nunca ha claramente por la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo siempre ha tratado de ensuciar el ambiente y a través ya digo de acciones omisiones o declaraciones en fin venir aquí a defender la teoría del conflicto político según la cual

existió pero fue simplemente una más de las muchas violencias que hemos sufrido en euskadi de la actitud de eh bildu no tengo nada que decir simplemente decir que es absolutamente repugnante y que vuelve a hacer gala de un cinismo político absolutamente insoportable pero es que es la actitud del partido nacionalista vasco la que vuelve a ser

de nuevo debo traer la frase de maite pagaza que creo que define la actitud del partido nacionalista vasco y de este gobierno perfectamente en relación a esta cuestión

para que no haya ninguna víctima todas las víctimas para hacer desaparecer a las víctimas de eta para diluirlas en un océano de maldades para contentar a la izquierda abertzale en su pretensión de lavar historia es decir su apoyo histórico a eta ustedes se comprometieron aquí pomposamente a acercarse a las víctimas del terrorismo pero hoy vuelven a darles la espalda y creo que efectivamente con este lehendakari y con jonan fernández en un secretaría que se llama de paz y de convivencia no se puede esperar ya

a ustedes les obsesiona seguir defendiendo la teoría del conflicto político de ahí su propuesta de mezclar lo que no puede mezclarse

de las víctimas del terrorismo efectivamente modifican el mapa de la memoria del mismo modo que se manipuló el día

no llego a entender aceptó porque el día de memoria tenía como objetivo inicial literalmente

de un tiempo de convivencia basado en el respeto la libertad y la responsabilidad

singular en la que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas podamos conmemorar el recuerdo

arrebató sus vidas bien esto se modificó y ahora ustedes modifican el mapa de la memoria sin consenso y presentan la reformulación del mapa de la memoria

comparece en el parlamento vasco para presentar su mapa del terror qué casualidad primero

el día de la memoria luego se distorsiona y se modifica el mapa de la memoria ya sabemos con qué objetivos etaren biktimak beste biktimekin

rompe los consensos rompe otra vez los consensos para que ustedes puedan acercarse al mundo que sigue sin condenar a eta lo que hace es difuminar

el terrorismo de eta en un ambiente de violencia de todos contra todos donde eta aparezca algo así como una especie de violencia defensiva mezclarlo todo

es una grave equivocación y ustedes inciden nuevamente en fin ya digo una iniciativa que se presentaba con la pretensión de unir a todos los partidos políticos democráticos en algo absolutamente fundamental y perfectamente razonable que seamos capaces de poner en primera línea a las víctimas del terrorismo de homenajearlas

ni eso ya es posible en este parlamento puesto que el partido nacionalista vasco vuelve otra vez a unirse a eh bildu eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta yo vuelvo a decir no la iniciativa presentada la enmienda de transacción

es una enmienda de transacción limpia es que es una enmienda indiscutible es perfectamente ejecutable por los ayuntamientos y asumible es decir es de

cuestión de justicia yo creo que está claro mire señor iturrate trabajen ustedes por las víctimas del terrorismo y también por otras víctimas pero no las mezclen

no mezclen esas realidades en planes no mezclen las estrategias políticas en relación con las víctimas cuales quiera que sean no lo hagan

aprobado por la secretaria del plan de paz y convivencia que ha asumido el lehendakari como el otro día me respondía a una pregunta culminando el mapa de la memoria sugerencias para desarrollar en el ámbito municipal actuaciones de memoria y reconocimiento

la calidad de las actuaciones políticas y lo debe de hacer y lo tiene que hacer la verdad es que no ha dicho en su

con respecto a la enmienda de transacción no lo ha dicho

su grupo en san sebastián señor iturrate ustedes tienen que elegir lo han hecho ya bastantes veces últimamente tienen que elegir

para decidir está claro

haga por favor que no parezca que lo único que diferencia ahora en este momento político al partido nacionalista vasco y a eh bildu en la actualidad

porque todo lo demás les está uniendo últimamente señor iturrate hace poco hablábamos de rigor histórico en el análisis

con las víctimas del terrorismo quieren mezclarlas quieren diluirlas no nos parece justo

del terrorismo diluirlas con otras realidades también identificables que tenemos que valorar pero de forma por favor separada

y que se abstenga como hizo su grupo en san sebastián señor maneiro va a ser duro

estar en el mismo grupo europeo que el partido nacionalista vasco con las claves en las que se mueve últimamente le deseo mucha suerte y como siempre las palabras del señor arzuaga son tristes son

fue el gobierno del lehendakari patxi lópez del que formé parte el que sacó a

la que puso en marcha un decreto para atenderlas y reconocer sus reivindicaciones con rigor con mecanismos viables

en que se recuerde estamos empeñados en que la historia perdure de lo que ha pasado en este país

el gran problema es que en euskadi vamos a seguir recordando siempre que hubo gente que asesinaba y gente que fue asesinada

estaba en contra del terrorismo y gente que enfrente gritaba eta mátalos

todos los días para acabar con el terrorismo y asentar la convivencia

lógicamente quiere blanquear su pasado sí vamos a intentar que la historia perdure precisamente para que no tengan la posibilidad de blanquear su pasado de evolucionar y cambiar sí pero asumir las responsabilidades de su pasado también de mirar al futuro sí pero de no olvidar la historia y señor iturrate no me haga trampas en el argumentario usted ha dicho que comparten

que el gobierno socialista puso en marcha sí las ha citado el día de la memoria el memorial de víctimas del terrorismo el instituto de la memoria incluso

que no fue mérito solo del gobierno socialista lo hicimos buscando consensos con mucho esfuerzo como luego por cierto recordaré sabe cuál es el problema

esos consensos y esas políticas quieren cambiarlas y ese es el problema el problema es que quieren cambiarlas porque es muy fácil usted dice que quiere avanzar el problema es que ustedes solamente quieren avanzar en el camino que ustedes indican sin ponerse en el lugar del otro y reconocer que igual los demás no queremos avanzar en esa dirección y dice que quiere consenso por centrarnos en este punto en concreto mira es muy fácil retira usted de la enmienda una palabra dos dice el texto

y es muy fácil el consenso nos sentamos ahora mismo y recomponemos todos los consensos del pasado y mire le voy a pedir que le trasmita al secretario general de convivencia porque me dijo

que no había documentos sobre lo que había sido el origen del mapa de la memoria y le diré que le emplazaré

documento uno que se relea la comparecencia de quien habla en su primera intervención como consejero en esta cámara documento dos que se lea

dos mil once y dos mil doce donde se dice con absoluta claridad en todos ellos queremos poner en marcha un nuevo proyecto el mapa de la memoria para que marque puntos en euskadi donde la lacra terrorista sembró de dolor y destrucción para que se recuerde a las víctimas del terrorismo documentos

también como consejero presentando los presupuestos documento de comparecencia a petición del señor maneiro para explicar los retrasos según él

el mapa de la memoria comparecencia en pleno y comparecencia en comisión donde se dijo con claridad hablamos de un mapa de la memoria de víctimas del terrorismo de todas las víctimas del terrorismo y tampoco me haga trampa en relación con el día de la memoria porque uno

y mire el día de la memoria se suscribió en un documento el veinticuatro de mayo del dos mil diez lo firmaron arantza quiroga el presidente de juntas generales de álava el señor antonio zarate

de gipuzkoa rafaela romero el presidente de eudel

y quien le habla como consejero de interior y en ese documento

digo para que se lo lean en el que también se dice con claridad que el mapa de la memoria es para recordar a todas las víctimas del terrorismo

se deja muy claro lo que se quiere perseguir con el mapa de la memoria

mire ustedes tienen una decisión que tomar hoy y me parece que es una decisión trascendente que es si quieren hacer un esfuerzo para mantener los consensos que construimos juntos en el pasado o quieren construir otros consensos con otros

es una decisión que tienen que tomar pueden con toda legitimidad tomar la decisión de que consensúan con eh bildu y votan esta iniciativa con ellos ahora también para ser claros yo siempre lo soy le diré tomamos nota yo le rogaría que retirara su enmienda

que la mejor política también en memoria es aquella que se hace desde el consenso y aquella que se hace desde un consenso sustentado en valores éticos

y si usted es coherente con su intervención en relación con eh bildu debería pensárselo debería reflexionar sobre lo que hace con su iniciativa y acabo medio segundo simplemente recordar que cuando aprobamos la ley de victimas de terrorismo en esta cámara el señor oskar matute

si es una buena ley lo que estamos discutiendo hoy en relación con el mapa de la memoria es consecuencia clara y llanamente de esa ley

señora presidenta no voy a estar repitiendo lo que venimos repitiendo durante años

en la justificación de la teoría del conflicto jamás hemos justificado la necesidad ni el valor ni la importancia ni la existencia de eta desde sus inicios jamás ni hemos

ni nuestra actuación por activa o por pasiva ha dado pie a que nadie pueda pensar o mantener que la lucha de eta estaba justificada por la existencia de un conflicto político y quisiera recordarle señor maneiro que cuando en el año mil novecientos setenta y ocho el pnv llamaba en solitario por primera vez a la ciudadanía vasca

alguno de los representantes públicos de upyd en aquellos momentos estaban militando en algunas de las múltiples ramas u organizaciones de eta

lo que quiera pero nuestra postura nuestra trayectoria en todo este tema

todo este tema ha sido limpio y claro y claro frente a eta desde sus

jamás hemos insultado a las víctimas jamás hemos pretendido ofenderlas cuando hemos reconocido y hemos

por momentos de olvido que haya podido haber pero jamás hemos ofendido y hemos insultados a las víctimas

ustedes ahora con las víctimas asesinadas injustamente en nombre de la razón de estado porque

dice que cuando nosotros mezclamos víctimas nosotros no mezclamos víctimas nosotros reconocemos

los mismos derechos para las víctimas de la violencia política en euskadi y para las víctimas del terrorismo los mismos derechos que la legalidad internacional reconoce

de justicia y de reparación y por lo tanto es ese nuestro camino

tenemos para elegir nosotros elegimos la postura del partido nacionalista vasco que es firme desde los inicios de eta elegimos estar con la verdad con la justicia y con la reparación elegimos estar en la defensa de los derechos humanos y elegimos ratificarnos

de la legislatura pasada lo que se ha venido en llamar el suelo ético

para la construcción de la convivencia y en eso estamos empañados y mire nosotros no queremos cambiar ningún camino señor ares ningún camino que no hayamos andado juntos

ustedes tendrán que explicar porque han dado un parón en un camino que empezamos juntos y que ustedes unilateralmente cuando dieron el portazo en la ponencia de paz y convivencia en esta legislatura todavía sin explicar pero no explicada todavía sin explicar ustedes dieron un viraje y rompieron un camino de consenso que habíamos condensado juntos ambos cuando

con gobiernos anteriores pero también cuando usted estaba con la responsabilidad de la consejería de interior del departamento de interior en el gobierno vasco y en el que este grupo parlamentario actuó con una lealtad

que creo que fue absolutamente irreprochable y que me gustaría observar hoy también

mire es verdad que el día de la memoria que el mapa de la memoria estuvo como objetivo honrar a las víctimas del terrorismo

también señor ares nació con ese objetivo el día doce de septiembre de dos mil once

el parlamento vasco insta a las instituciones firmantes de la declaración del día de la memoria celebrado el pasado año a mantener el espíritu por el que se estableció dicho día mantener la memoria de todas las víctimas de terrorismo recogidas en la ley

y seguía siendo conscientes habían pasado dos años siendo conscientes de que los años de actividad criminal de eta han existido otras víctimas inocentes además de las contenidas en la menciona ley y recogidas en la proposición no de ley

por todo ello insta a las instituciones antes mencionadas a que de forma progresiva y conforme vayan siendo reconocidas por el gobierno vasco se incorpore su memoria en la conmemoración del diez de diciembre desde esa fecha señor ares

asesinadas y yo le pregunto no tienen derecho a un sitio en la memoria colectiva en el mapa de la memoria y ya que usted

acto de contrición que es verdad que fue bajo su gobierno pero que fue impulsado por una proposición no de ley presentada por la señora ezenarro digo por dar a cada una lo suyo porque estaba usted haciendo un ejercicio de reclamación de paternidad que para sí quisiera quien ha presentado una demanda por cierto

ya no rey o rey honorífico en el estado mire

el de avanzar en el camino de una memoria inclusiva e integradora ese era el discurso del señor loza en la legislatura pasada ese era el discurso cuando ustedes con nosotros se negaban a debatir las proposiciones no de ley que traída el señor maneiro a la cámara lo que no sé qué es lo que ha pasado de entonces a ahora probablemente que usted ya no se sienta ahí

por lo tanto si vamos a exigir responsabilidades vamos a mirarnos primero cada uno a nuestro interior así fue

para eso extendemos la mano al acuerdo señor barrio

porque sabe usted el gobierno central el gobierno que preside mariano rajoy no ha hecho nada todavía en tres años para poner en marcha el memorial de las víctimas del terrorismo nada el mes pasado no había un solo papel todavía escrito un proyecto

de las víctimas del terrorismo señor barrio obras son amores obras son amores dejen de utilizar a las

una iniciativa a favor de las víctimas del terrorismo y dice que es porque no aceptan ser mezcladas con otras supuestas víctimas

hori dela guk onesten dugun bidea eta hori da guk bultzatuko duguna se lo he dicho y no he tenido respuesta por parte de ninguno me parece pura hipocresía hablar de colocar placas o cualquier otro elemento memorialista de aquellos que nos interesan mientras se responde con iniciativas de delegado del gobierno por medio de exhorto de tribunal si no es por medio directamente

para denegar memoria a aquellas víctimas que nos resultan incómodas que no nos interesan simplemente exigimos respeto en igualdad a todo sufrimiento para establecer la verdad y la justicia porque es cierto que en algunos casos ha habido una administración activa y reactiva

no ha existido unas han sido víctimas y otras resulta ser eso las otras víctimas y señor ares usted parece que entra en cambalache suprima la palabra violencia y le apoyaremos bueno no parece que está usted muy contento parece que reniega de esa presunta paternidad que tuvo

abre el camino y que debe de continuar porque nos queda todavía mucho

sin embargo no quiere hablar de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sean del color que sean esas denominadas eufemísticamente otras víctimas esas de abusos policiales que por no tener no tienen ni siquiera apoyo en una normativa

legal para verse reparadas y se tienen que remitir a un decreto que por cierto como se ha apuntado estáimpugnado por el estado

iba demasiado lejos ustedes abandonan a las víctimas a ciertas víctimas no existen para ustedes

por establecer derechos iguales para todas las víctimas porque cierto que nos queda todavía mucho trabajo para hacer atendiendo a algunos números que se ponen sobre la mesa

números que todavía desde nuestro punto devista no están lo suficientemente verificados y que sin duda aportaremos casos más allá de los ya aportados y de los ya verificados en este informe de base permítame que recuerde

por el estado con fondos públicos y fondos reservados ese terrorismo que ha supuesto saber que llegarán con nocturnidad y alevosía detendrán incomunicarán y para seguir con el protocolo torturarán algo que lamentablemente

y se ha verificado que todavía es dramática actualidad hoy en este país por mucho que a ustedes no parezca interesar tratarlo

si mis palabras son irrelevantes pero usted debía de apoyar sus palabras y debía de apoyar su iniciativa en las palabras de un rey
de un rey extranjero qué quiere que le diga gora euskal errepublika eskerrik asko arzuaga jauna

decía que su iniciativa es extemporánea en lo referente a la ope

porque quiebra el principio de seguridad jurídica y yo creo que esos son sí

usted ahora a dicho que no le parece tan importante esta oferta pública de empleo pero en el texto de su iniciativa la vinculaba directamente a la oferta pública de empleo que se ha realizado ahora hombre si se ha realizado de una manera se tiene que mantener de esa manera es un principio de seguridad jurídica

la convocatoria está hecha se han generado unas expectativas y se mantiene

y desde luego lo que más me llama la atención también es que usted hace la iniciativa entiendo que convencido de las bondades de la misma pero desde un desconocimiento absoluto

y del uso que la ertzaintza hace del euskera y de lo que opinan los trabajadores

porque es un consenso generalizado entre ellos que entre el sector el pl dos es un nivel de exigencia excesivo y lo dicen todos

no se puede ignorar y entiendo que esta iniciativa obedece a sus intereses y a sus objetivos políticos y yo entiendo el interés que tiene usted de que todos los servicios de la administración pública se hagan en euskera todo lo relacionado con lo público y ahí estamos de acuerdo nosotros también es una obligación y es en una comunidad bilingüe con dos idiomas oficiales por supuesto pero como le decía

real del cuerpo de policía vasco por lo tanto nosotros abogamos porque la ope se quede como está por razones de legalidad y de oportunidad y lo que sí queremos

hablar hoy en el pleno es sobre la necesidad de que con la experiencia

y con muchos informes y muchos planes de normalización lingüística abordemos un análisis

de comunicación oral para dar ese servicio a los ciudadanos pero también dentro de la administración y con otras administraciones cuestiones que ya hemos debatido en esta cámara

por lo tanto esa es una tarea que creemos que hay que abordar y que además es oportuno abordarlo en esta legislatura porque no es una tarea fácil ni es una tarea de hoy para mañana

se realizan esas funciones y con qué frecuencia realizan los trabajadores cada una de sus funciones de su puesto de trabajo con los idiomas a la hora luego

a ese puesto de trabajo y otro de los factores también que hay que tener en cuenta y que a veces se olvida a la hora de asignar los perfiles lingüísticos es la adecuación de los perfiles a las características socio lingüísticas

de la ertzaintza porque están desplegados en todo el territorio vasco pues hombre cobra más importancia que en ninguna otra ocasión por lo tanto

por lo tanto la propuesta de los socialistas que quería poner hoy de manifiesto porque creo que viene al caso y además es un sector especialmente sensible con este tema es que es el momento de que el gobierno vasco política lingüística analice los puestos de trabajo y diferencie

que la ertzaintza que justicia que administración general que

de una manera muy diferente porque en realidad cara al público

y poco más en lo que sería administración general por lo tanto nosotros abogamos por una revisión de los perfiles y explorar incluso una cuestión que tiene sus dificultades lo reconozco que sería la elaboración de perfiles mixtos es decir diferentes niveles

los perfiles se hicieron un poco a troquel estos son los perfiles sirven para todo y además tenemos que tener el mismo nivel de habilidad en oral en lectura y creo que no es lo mismo no es lo mismo por lo menos en todos los puestos de trabajo

que un cirujano o que un asesor jurídico del departamento de justicia por ejemplo por lo tanto todas esas cuestiones yo creo que con la evolución de todos estos años sería razonable tenerlas en cuenta y tratar de avanzar hacia un sistema de esos porque en definitiva de lo que se trata es de dar un buen servicio a la ciudadanía

que la oralidad prime sobre lo escrito y se hace también fundamental adecuarse a la actividad laboral porque también otra de las cuestiones que la ertzaintza acusa mucho es la desmotivación estudiar estudiar y estudiar y que al final veas que

yo creo que focalizar también que lo aprendido resulte practico para que los ertzainas luego lo puedan utilizar

en sus labores diarias en la relación con la ciudadanía y luego no hay que perder de vista también las especiales características y circunstancias en que

hoy vivimos un momento muy diferente pero hasta hace dos días

que son un número cerrado no podían ser liberados de su puesto de trabajo para aprender euskera porque eran insustituibles y en algunos puestos más insustituibles todavía entonces había muchos que con mucho esfuerzo en algunos puestos de trabajo

pero sin ninguna ayuda y sin ninguna liberación y eso también hay que ponerlo de manifiesto a la hora de analizar la cuestión no es como el resto de la administración son otras personas muy especiales y luego también hay que recordar la dificultad que también tenían muchos ertzainas cuando iban a los euskaltegis no en todos los euskaltegis eran bienvenidos los ertzainas cuando se conocía que eran ertzainas

a la hora de establecer obligaciones como las que usted quiere poner en esta iniciativa que ha traído a esta cámara de elevar el nivel

en cuenta también todas estas cosas son las que han ido bueno que tengamos la foto que tenemos ahora mismo

en su discurso que es que cada vez las generaciones nuevas

con un nivel de euskera suficiente como para tener una comunicación aceptable con la ciudadanía yo diría con carácter general y esa es una buena noticia paulatinamente vamos a tener nuevas generaciones nuevas

que van a conocer el idioma pero luego también

hay que poner de manifiesto también otra peculiaridad que se da

se da en general en toda la administración pero se nota específicamente en interior y es que

es donde se considera que son como comisarías de paso por la que

euskera el idioma el perfil como mayoritariamente son vizcaínos

donde realmente la atención al público no se hace tanto en euskera como se puede hacer en gipuzkoa se hace más en castellano y nos encontramos siempre con ese gap que bizkaia

bilingües que en gipuzkoa donde realmente socio lingüísticamente

sí requiere el conocimiento del euskera y todas estas dificultades y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de abordar esas cuestiones

a la hora de analizar estas cuestiones y proponer hay que hacerlo pensando también en una graduación

consideramos que recoge no solo la obligación legal de atender en euskera y en castellano y de seguir trabajando para conseguirla sino que

o mejorar los aspectos orales sobre los escritos primero para no generar frustraciones en los ertzainas segundo para atender mejor a la ciudadanía porque realmente

para que puedan hablar con los ciudadanos en la lengua que estos elijan no solo para cumplir la ley que a veces pasa en la administración y esto que hoy estamos hablando con respecto a la ertzaintza lo mismo vale para osakidetza o lo mismo sirve para la administración general

lo deseable es que el euskera sea un idioma de uso en el puesto de trabajo y en las relaciones interpersonales

estas son las razones por las que hemos firmado esta enmienda transaccional y era el espíritu de nuestra enmienda por lo que no
compartimos el espíritu de su iniciativa original nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

gracias presidenta el señor isasi se ha hecho un pequeño lío en su justificación de su iniciativa no tuvo su día se equivocó todos nos equivocamos yo

ustedes se confunden los perfiles lingüísticos existentes

el pl uno de la ertzaintza corresponde al pl dos de la administración y el pe ele dos de la ertzaintza es básicamente

es decir han presentado una proposición no de ley sin tener ni idea de qué están hablando y ya se lo han dicho sin conocer internamente

sin conocer su historia y sin conocer sus características propias claramente diferenciadas por cierto exigir

creo que llega a proponer el requisito del ega

que no sé si es exactamente lo que usted pretende es decir que al día siguiente de que se aprobara lo que usted propone

prácticamente nadie aprobaría el

además de un exceso por lo tanto puro surrealismo y piden en la justificación que se exijan perfiles lingüísticos tres y cuatro en los puestos que corresponda cuando no existen tales perfiles lingüísticos para la ertzaintza oficialmente

o tienes el ega nada más ni siquiera ha habido examen de pl dos si lo hubiera

ya digo que el pl dos de la ertzaintza viene a ser el ega por lo demás

proponer eh bildu ya digo porque todo el mundo podría equivocarse y

si vamos al asunto político de la cuestión y lo que

en fin si lo que pretende defender es que todo el que quiera ser ertzaina deba tener el ega

no estamos de acuerdo en absoluto y conociendo las obsesiones lingüísticas del proponente no dudamos de que su objetivo es ese si por el señor isasi fuera

no podría acceder a ningún puesto de trabajo de la administración obviando la realidad lingüística de euskadi

obviando que no puede discriminarse a nadie gratuitamente por razones lingüísticas obviando que no puede exigirse a todos los trabajadores de la administración

independientemente del puesto de trabajo en el que se sitúe y mucho menos de un día para otro en fin obviando todo aquello que cualquier demócrata entiende

yo creo que basta para entenderlo vivir en euskadi y conocer no ya la historia reciente de nuestra comunidad sino sobre todo cuál es la realidad social y lingüística actual en la que nos movemos

si solo una parte de la población lo conoce y muchos menos lo hablan en su día a día para nada y no digamos ya que todos tengan o deban tener un nivel de ega propuesta alejada totalmente de la realidad la imposición lingüística no está en absoluto justificada por mucho por cierto que el euskara sea lengua oficial hay que tener en cuenta que fue calificada como lengua oficial cuando muy pocos la conocían y hay que tener en cuenta ya digo la realidad social que muy probablemente no cambie en años o en décadas o incluso nunca es posible que el euskara vaya a tener un peso limitado

en el mundo globalizado actual es lógico que el castellano termine imponiéndose

no pasa nada por ello no hay que forzar a toda una sociedad a reconvertirse lingüísticamente relájense

arnasa hartu eta lasaitu respire hondo y no se preocupe por los conocimientos lingüísticos del resto de la ciudadanía tranquilo

usted obsesionado con este asunto quiere reciclar a la sociedad de un día para otro quiere que

señor isasi conozca cuál es la realidad muévase por las diferentes partes de euskadi hace veinte años había un quince por ciento de la población que hablaba euskera hace treinta un diez por ciento tranquilo la gente ya va a aprendiendo los niños ya van hablando

lo que nosotros en fin proponemos en nuestra enmienda es que se exija euskera a quien realmente lo necesita para realizar óptimamente su trabajo tal como hemos señalado en otras ocasiones

que tener unos conocimientos en euskera que no necesitan en absoluto para realizar perfectamente su trabajo yo creo que sus propuestas y su

responden a una obsesión que no se corresponde con la realidad lingüística de euskadi que expulsaría a centenares de miles de ciudadanos del acceso a la policía vasca supone simple y llanamente un atropello lingüístico absolutamente inaceptable y un nuevo exceso que nosotros rechazamos contundentemente de ahí nuestra

sin haber hablado con nosotros pero en la que proponíamos que el parlamento inste al departamento de seguridad del gobierno vasco a establecer

para el correcto desempeño de las tareas a desarrollar en el correspondiente puesto de trabajo creo que es bastante razonable lo que nosotros pedimos por lo demás señor isasi quiero recomendarle un texto y un libro

pero le recomiendo el artículo lengua y secesión política lingüística y futuro en el país vasco de matías múgica incluido en el libro la secesión de españa que seguramente no le gustará pero que le vendría muy bien poder leer todo él es una verdadera joya donde es difícil destacar algo usted que es un ávido lector y no solamente en lengua vasca seguro que

y pueda adquirir este libro y lea este artículo yo se lo pido que lea este artículo quizás yo destacaría esta frase que se convierte en consejo personal que yo le hago a usted habitualmente preocupado por estas cuestiones lingüísticas

esto creo que no iba pensado en usted cuando escribió esto pero creo que nos vendría bien a todos y especialmente a usted señor isasi hay que elegir

donde la perduración del euskera sea desgraciadamente incierta y otra sometida a intervencionismo control social e injerencia totalitaria

organización muy del gusto de la legión de curas y ex curas

y que quizás preservaría el euskera mi elección es clara cuál es la suya señor isasi gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos

una cuestión relacionada con el euskera en este caso bildu nos plantea que para la convocatoria de acceso a las

como mínimo el perfil dos para todos los aspirantes y se podrá estar de acuerdo o no pero desde este grupo no estamos de acuerdo y por eso no habíamos presentado enmienda alguna porque íbamos a votar

además antes de plantearse si se está de acuerdo o no sobre esa exigencia del pe ele dos a juicio de este grupo se parte de un error

como es la diferencia entre los perfiles pero es que además

porque ustedes llevan a cabo una serie de afirmaciones como si de verdades absoluta se tratara y obviando la verdadera realidad no vamos a poner en duda

la atención de la ciudadanía que así lo quiera en euskera eso no implica que todos tengan que saber euskera que todos

quien tiene garantizado a ser atendidoen euskera es el ciudadano pero no

que saber euskera porque además usted en la iniciativa aunque luego aquí lo ha intentado corregir hablando de policía de proximidad

que es una necesidad absoluta para el desarrollo de su labor pues bien la ley de policía vasca establece en su artículo tres cuál es el cometido y función principal y su cometido

a cuyo efecto deben velar por la pacífica convivencia y proteger a las personas y sus bienes de acuerdo con la ley por tanto no hace falta ser un experto policial para darse cuenta de que la principal función de la ertzaintza como cuerpo policial es garantizar

y para desarrollar esta labor desde luego es cierto que algunos puestos

tener un conocimiento del euskera pero desde luego no es un requisito imprescindible

para ejercitar esa labor encomendada si un ciudadano sufre un robo con fuerza en plena calle una intimidación un asalto a una vivienda creame sinceramente

va a ser que se resuelva que haya una resolución probablemente también

que con una entidad inferior a que se resuelva realmente ese delito que ha sufrido por lo tanto lo primero ya se lo han dicho otros grupos

y dejar de lado planteamientos políticos y ajustarlos a la realidad y a las necesidades de la ciudadanía

y sobre todo la realidad socio lingüística de nuestra comunidad autónoma

esconden un planteamiento estrictamente político pretenden instalar esa política lingüística basada en el café para todos sin tener en cuenta ni la realidad ni la idiosincrasia lingüística tan dispar en muchas ocasiones en nuestra comunidad a nuestro juicio a la hora de planificar política lingüística se deben de tener se lo han dicho otros grupos en cuenta las demandas y las realidades y debe primar el principio de la racionalidad y sobre todo de la proporcionalidad no podemos pasar por alto como lo hacen ustedes deliberadamente las singularidades las peculiaridades las especificidades y las particularidades lingüísticas de cada localidad entendemos que es necesario a la hora de planificar una política lingüística razonable y adecuada

además de ver cada puesto de trabajo y las funciones que cada uno tiene el llevar a cabo

y un mapa en función de todo lo anterior porque no me negarán que poco o nada tiene que ver la realidad socio lingüística y por lo tanto la demanda de atención en euskera

no me podrán negar que la utilización del euskera es muy dispar en la comisaría de ondarroa o azkoitia de la que puede ser en la comisaría de sestao

por ello tampoco pueden ser similares ni los ritmos de extensión ni las exigencias en torno al euskera el euskera junto con el castellano

pero el idioma debe ser entendido como un instrumento de comunicación como una herramienta de integración

como un elemento de exclusión y de confrontación ustedes y sus antecesores políticos han hecho del euskera una reivindicación estrictamente política

que todavía ponen más de manifiesto el carácter político de su iniciativa y no será este grupo quien presente

antagonismo entre el euskera y el castellano ya que para este grupo parlamentario ambas son nuestras lenguas y son y deben ser instrumentos lingüísticos complementarios el euskera ha sufrido una evolución positiva en los últimos años probablemente podría haber sido mejor son cada vez más los vascos que lo conocen y lo domina y en el futuro

los ritmos y las realidades ya que las precipitaciones y las ansiedades lingüísticas no son buenas consejeras señor isasi las políticas de cazador en vez de generar apegos

lo que hacen es favorecer la disensión en materia lingüística y otros grupos lo han dicho aquí las posiciones maximalistas las defensas del todo o nada que es lo que hacen ustedes urgencias o las impaciencias sustentadas en planteamientos exclusivamente políticos producen situaciones que lejos de impulsar el uso del euskera lo que hacen es retroceder y bloquear el avance del mismo usted ha nombrado elebide pues bien elebide que es como usted ha dicho el organismo oficial que recoge las denuncias o quejas por supuestas vulneraciones

la verdad es que la realidad no parece apuntar a lo que ustedes siempre pretenden trasladar durante el ejercicio dos mil trece se recibieron trescientos cuatro quejas por supuestas vulneraciones de derechos lingüísticos por parte de la administración pues bien pero si comparamos esto con el número de consultas recibidas o con el número de quejas recibidas

las supuestas vulneraciones representan el cero coma seis por ciento este porcentaje sería aún menor

que atienden el conjunto de todas las administraciones públicas no solo del gobierno vasco en todos y cada uno de sus departamentos todos estamos de acuerdo en una paulatina euskaldunización no solo de la ertzaintza que es verdad y además ellos han puesto de manifiesto todos los sindicatos

y la han tenido en el pasado y la señora mendia le ha dado las razones para ello

hay que ir a la progresiva y paulatina euskaldunización del conjunto de la sociedad

dos principios fundamentales la progresividad y la proporcionalidad ni podemos ni debemos establecer exigencias no fundadas camufladas bajo falsas apariencias y necesidades imperiosas

alejados desproporcionados y desajustados a las realidades sociolingüísticas existentes

no somos amigos de los antagonismos lingüísticos creemos en la complementariedad en la convivencia normalizada en el avance progresivo en el respeto mutuo y en el sentido de la proporción creemos en la despolitización del euskera en su no utilización como arma e instrumento político como hacen ustedes

de quererlo y entenderlo no en las atribuciones exclusivas la uniformidad la homogeneidad

único en materia lingüística flaco favor hacen al propio euskera ustedes que tanto les gusta y tanto dicen defender la palabra la ciudadanía vasca

escucharle que está a favor de darle una vuelta a la política lingüística bien bueno pues tenemos ese reto que yo he lanzado encima de la tribuna

después de tantos años de política lingüística políticas de normalización en la administración en los diferentes sectores si queremos caminar más allá de cumplir la legalidad

en sus preocupaciones entiendo con buena voluntad lo que quiere es avanzar por encima de la legalidad es decir qué queremos en definitiva que se use el euskera

los perfiles y la adecuación de los perfiles a los puestos de trabajo porque de nada sirve que los funcionarios que tengamos adquieran el perfil si luego no lo usan una de las cosas que trabajamos en el gobierno

fue realmente la política de traducciones del gobierno porque era una paradoja increíble que nos encontrásemos con cantidad de funcionarios que eran bilingües que tenían el perfil acreditado y sin embargo no lo usaban en su puesto de trabajo y al mismo tiempo la administración se veía obligada a gastar un montón de miles de euros en traducciones

de qué política de traducciones oficiales tiene que tener el gobierno vasco

muy bonita para hacer y que creo que además tenemos la obligación de abordarla y soy consciente de la dificultad que entraña esto para el gobierno pero creo que es el momento adecuado para que desde política lingüística empiece a hacer una tarea con todos los departamentos del gobierno con los diferentes sectores analice

encargado por el gobierno socialista y presentado por la actual consejera de educación y cultura de evaluación de los perfiles lingüísticos

bastante claras y yo recomiendo la lectura de dicho informe a todas las personas de esta cámara que estén interesadas en el mismo y partiendo de esa realidad que además está hecha con los funcionarios y los trabajadores del gobierno ver cómo se puede avanzar

con todas sus peculiaridades hay que tenerlo en cuenta

más allá de que también lo hagan en euskera en aquellas zonas donde tengan que hacerlo

pero también cuentan que en comisaría tienen a veces necesidades de hablar otros idiomas porque tenemos nuevos ciudadanos entre nosotros que hablan otras lenguas luego en fin las necesidades
en interior en las comisarías son muchas y muy variadas muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

gracias señora presidenta señor isasi es que me reitero total y absolutamente

en la primera intervención que he hecho porque usted ha sido incapaz de contestar

o de fundamentar la petición que ponía de manifiesto en la exposición de motivos de su preposición no de ley es decir

por qué según usted para ejercitar la labor

debe tener el pe ele dos es que ha sido incapaz ha sido incapaz más allá de esa reivindicación política

más allá de eso ha sido incapaz y yo le he dicho por qué ha sido incapaz porque es que es indefendible el otro día

que para llevar a cabo esa labor en absoluto es un requisito imprescindible

y porque se lo han dicho aquí el orden público y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos es la base

de las obligaciones de la ertzaintza de la labor que tienen que realizar

con que sea con esa posibilidad

pero es que tiene que ser proporcionado y es que en absoluto para ejercitar

es un requisito imprescindible que todos y cada uno de ellos tengan acreditado el perfil dos y además le digo una cosa y se lo han dicho aquí también en muchas ocasiones como

después de la política lingüística llevada a cabo por gobiernos anteriores y en algunos casos responsabilidades

se diseñó una política se gastó muchísimos fondos públicos y según usted es un fracaso y es verdad que es un fracaso

porque ustedes lo conciben como un instrumento político lo conciben como una imposición porque ya han llevado a cabo la política del cazador y eso lejos de motivar

muchos funcionarios aprenden euskera porque le da más posibilidades

de acceso pero no hay una motivación y por eso luego no se utiliza porque lo ven como una imposición por eso la política lingüística no ha funcionado

en su vida cotidiana y entre ellos porque está diseñada la política ya le digo como el café para todos sin tener en cuenta la zona

y eso es lo que ha llevado a lo que ha llevado le voy a decir muchos agentes

de lo contrario de que requisitos que son necesarios para la capacitación y para realizar mejor

están infinitamente peor valorados que el euskera como por ejemplo conocimientos que el otro día hablábamos o licenciaturas en carreras superiores como puede ser derecho o psicología que en algunos casos son necesarios

el conocimiento de otros idiomas que como se ha dicho teniendo en cuenta

en algunas zonas eso no está valorado está infinitamente pero valorado que el euskera en la carrera profesional la hoja de servicio que en otras policías se valora aquí no se valora y evidentemente es muy importante

si un agente ha estado siempre en un sitio atendiendo al público sí

o si ha estado ejerciendo otro tipo de labor y eso no se valora se valora infinitamente más el euskera con lo cual

es las necesidades para ejercitar esa labor y si es necesario

no es así y desde luego esa política lingüística diseñadas por